eman beharreko pausoak emanez no creo que pille de sorpresa a nadie si les digo

martes día quince de octubre en el boletín oficial del país vasco el martes día quince

sobre operaciones de cierre del ejercicio dos mil trece esto es algo que ustedes conocen todos

para dos mil trece con los mismos recursos ya me dirán qué sentido tiene veo también que se ha corregido el error de planteamiento que hacía

inicial en el que mezclaba dos conceptos diferentes y en cuanto a la tramitación de la orden de financiación

precisamente para que los centros no tengan problemas con las obras que tenían previstas como se ha dicho aquí es decir que

problemas con dineros que hayan reservado hayan puesto a disposición de obras etcétera y en cuanto

una planificación de inversiones pues entonces veremos no o para qué piden una planificación de inversiones si ya están adelantando el contenido pues entonces no tiene mucha lógica esperemos a ver la planificación y entonces veremos

honetarako bueno pues yo a este respecto tendría que decir que el plan de inversiones

pero hacer un estudio del estado de conservación en seis meses de unos quinientos setenta edificios

realmente imposible salvo que tengamos que dedicar unos medios espectaculares

la transacción que veo que van a aprobar ustedes por una parte es de imposible cumplimiento legal por lo que he dicho de la orden de cierre y por otro lado tiene una parte de incumplimiento temporal sí podría ser cumplimiento la parte del plan de inversiones pero bueno es lo que tenemos eskerrik asko

sobre todo para las corporaciones municipales la orden de cuatro de julio de dos mil doce

destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de las administración educativa

fue la última la última esta era la orden de una serie que se repetía como ya se ha dicho aquí

no fue fácil conducir la cooperación entre el gobierno vasco y los ayuntamientos o las corporaciones municipales a un equilibrio de sesenta cuarenta el programa udalaguntza se llegó a llamar más conocido por sesenta cuarenta

el gobierno ponía sesenta el ayuntamiento cuarenta y generalmente siempre se producía la tensión en la que los ayuntamientos querían más

esos lugares municipales de propiedad municipal tienen muchas necesidades señorías

muchas necesidades y además son de alguna manera parcialmente

financiados por los ayuntamientos cuando alojan centros educativos dependientes

está en bastante revisión bien como digo fue la última porque ciertamente en el trabajo de control que nos ocupa que tenemos el agradable o desagradable de ver de hacer

cada día como digo resulta más difícil hacerlo puesto que el gobierno en concreto el departamento de educación ha adquirido una destreza inigualable en hacer que sus respuestas a las preguntas que formulamos no solamente no sean concluyentes sean inconcluyentes sino que además en muchas casos sean ininteligibles puede gastar hasta ocho nueve o diez líneas pero al final al punto final

al gobierno o el gobierno le debe al banco no tenemos ni idea y un ejemplo ha sido traído aquí por el señor oyarzabal concretamente esta pregunta es de antología una pregunta que formuló el grupo socialista yo misma en mayo bueno en junio

por otro lado en lo que respuesta dice estamos en este momento

que están encabalgadas de tal manera que un porcentaje se paga en el año

va en crédito de compromiso al año siguiente y este es el caso efectivamente quedaban ocho coma cinco millónes de euros para ejecutar en el dos mil trece que iban de crédito de compromiso

pero en dos mil trece no se ha producido ninguna orden de convocatoria que sirva para financiar

se nos anuncia por primera vez por parte del señor arieta araunabeña que la orden saldrá en diciembre

que la liquidación ya está hecha por tanto en fin a estas horas de la película no es que no sepan nada los ayuntamientos es que yo puedo afirmar que sus señorías

ni sabemos qué respaldo presupuestario habrá de tener lo único que tenemos es una anotación de seis millónes de euros para el presupuesto de dos mil catorce

con verdadero interés movido por la necesidad sin duda las corporaciones municipales esperan esta convocatoria año

precisamente movido por esa necesidad que tienen de que mejoren sus lugares para cobijar lo que es

tener ahí determinados cursos escolares generalmente en la educación obligatoria que están en los

esto es clarísimo es decir la infraestructura impacta de manera directa en la calidad de la enseñanza queremos tener un buen parque escolar

efectivamente en seis meses será muy difícil muy difícil llegar a aquilatar las necesidades de todos esos centros quinientos y pico que

pero no está mal establecer una orientación de la política que eso son en definitiva las proposiciones no de ley sino señorías

entonces realmente es una orientación de la política que sirve para trabajar que sirve para avanzar y por eso yo anuncio que

grupo parlamentario va a votar favorablemente a la enmienda de transacción

del grupo popular además he de decir que esto está presente

que ya desde la ley de la escuela pública vasca en la disposición adicional novena se recoge esta cooperación

entre el gobierno vasco y las corporaciones municipales para la creación construcción

de todas aquellas aulas o centros educativos que perteneciendo o siendo de competencia del departamento del gobierno vasco están alojadas

el apoyo de los grupos el grupo socialista también

agradecer ese apoyo que en principio pronostica que esta iniciativa va a salir a favor

va a salir aprobada por la mayoría de esta cámara simplemente para reiterar

ya expuestos y las conclusiones nosotros seguimos siendo partidarios y queremos defender hoy aquí esa colaboración entre los ayuntamientos

el equipamiento de centros de titularidad municipal para la reparación para el mantenimiento y para el sostenimiento de esos centros nos parece que eso es un empeño que no se debe descuidar

están esperando una respuesta del gobierno los ayuntamientos vienen realizando un esfuerzo y están esperando una respuesta del gobierno y necesitamos exigir esa respuesta del gobierno

que concrete cuáles van a ser las ayudas y el esfuerzo económico del gobierno

desde aquí también tenemos que decir no a los recortes en inversiones

creemos que tenemos desde aquí que pedir al gobierno un mayor esfuerzo en los recursos destinados a inversiones en centros educativos

infantil y primaria de titularidad municipal además desde aquí y sin ánimo de

esa petición al gobierno para la realización de ese estudio para conocer exactamente cuál es el estado actual

tiene que ser la previsión de necesidades de cara a la legislatura creo que es oportuno hacerlo y una vez que conocemos

lo que cabe solicitar al gobierno aquí está la consejera

que aunque no sea el pnv quien avale esta iniciativa

en aras de cumplirla nada más muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu anderea señor oyarzabal agradezco su agradecimiento

pero tal y como se lo he dicho en euskera también hubiéramos agradecido que usted nos hubiera llamado para firmar la proposición porque sabe perfectamente que estábamos de acuerdo con ella por lo que le respecta al señor arieta araunabeña me preocupa que le preocupe

cuándo viene la iniciativa y no el quid de la cuestión es decir usted nos está diciendo cómo traerla a día de hoy esto aquí cuando ya la ejecución

estamos hablando señor arieta araunabeña no de procedimientos

de temas como que en junio se fastidian los tejados o el tejado de un centro en lekeitio estamos hablando de que las ventanas

quiere hacer obras estamos hablando de que el ayuntamiento de renteria quiere arreglar también las calefacciones de eso estamos hablando es decir de posibilitar que los centros estén bien para cuando los alumnos y las alumnas vengan de eso es lo que estamos hablando

de lo básico de los centros por lo tanto le digo que es preocupante que usted se preocupe más del procedimiento y de cuándo se trae la iniciativa que de lo que realmente nos trae la cuestión eso por una parte por otra parte es la segunda en recortes en educación señor arieta araunabeña la semana pasada fue

las obras en los centros de educación primaria espero que el gobierno vasco no siga por este camino

y para acabar quisiera hacer también un comentario acerca de lo que usted ha comentado con el estado de los edificios no partimos de cero las delegaciones territoriales

hechos acerca del estado de los edificios de los centros de educación primaria les sugiero que pregunten a las delegaciones territoriales por otra parte se lo he dicho anteriormente también hay un plan plan dos mil nueve dos mil trece que planteaba a futuro cuáles eran las necesidades que había que abordar para que los centros

fueran de calidad y reunieran todas las prestaciones

para la docencia por lo tanto no es una cuestión

sino que ya hay información y yo creo que es una propuesta realista que se puede llevar a cabo lo mismo que se pide en la última parte y es que hagan un plan
a futuro para esta legislatura con respecto a las intervenciones que hay que hacer en los centros besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko empezando por el final me dice le preocupa cuándo viene en vez de preocuparle el quid de la cuestión no

es que me digan que para secarme me lance al agua eso es lo que no entiendo es lo mismo

por eso el gobierno lo que hace es lo que puede

con cargo a dos mil catorce precisamente para evitar que los municipios tengan problemas así de claro y por qué lo hace de esta manera

otros recursos y qué es lo que va a pasar a futuro pues a futuro pasará lo que salga en el plan de inversiones es lo que ustedes han pedido y lo que dicen y por qué digo estas cosas porque no es el gobierno el que

le fijan un techo de gasto el consejo vasco de finanzas y le dice usted tiene esto y arréglese con esto y luego

a donde van las partidas y claro si tenemos en cuenta que

a educación sanidad y bienestar social que ahora tenemos mayores problemas de empleo y ayudas sociales y encima tenemos

se presupuestó porque se entendía necesario porque no tendría sentido de que estando en crisis se hubieran presupuestado partidas que no sean necesarias

pues al final las cuentas son muy fáciles y dices oiga que de algún sitio hay que quitar

algo no llega es así de sencillo si esto no tiene mucho más misterio por lo tanto dicho esto qué es lo que hace el gobierno pues buscar seguir con un plan que había habido hasta ahora que era interesante y que consideramos

sino probablemente muy necesario y hacerlo de la mejor manera posible y hacerlo en función de los medios que tiene y es lo que está haciendo nada más y qué es lo que

por lo que se ha dicho dos cosas por una parte la propuesta

está bien que al parlamento oriente políticamente pero

puede ser un plazo flexible e incluso alguno de los grupos ha dicho que no es necesario ese estudio

que esta flexibilidad es muy de sentido común creo que todos participamos en que

esto es absolutamente necesario mantenerlo y en ello estamos e insisto se hace

lógicamente esperamos tener la colaboración de todos ustedes creo que algo de eso habrá tenido que ver también para que haya venido hoy y no hace cuatro meses esto aquí pero bueno que también creo que en ese sentido es de agradecer

lo cierto es que upyd desde el inicio de su presencia en el congreso de los diputados vino solicitando al gobierno de españa la presentación de un proyecto de ley de transparencia nacional lo hizo en varias ocasiones porque

era fundamental teniendo en cuenta además que españa era uno de los pocos países europeos quizás el único seguía sin contar con una ley de transparencia y de ahí las distintas iniciativas que planteamos en el congreso de los diputados para poder tener cuanto antes una ley de transparencia nacional una ley de transparencia digna de ese nombre hace aproximadamente año y medio

propio proyecto de ley de transparencia en el congreso de los diputados un proyecto que fue apoyado por todos los grupos de la oposición pero que fue votado en contra por parte del grupo apoya al gobierno a partir de ese momento el gobierno de españa presentó su propio proyecto de ley y efectivamente finalmente

una ley de transparencia nacional nosotros a este proyecto de ley de transparencia nacional presentamos la correspondiente enmienda de totalidad porque considerábamos que era una ley claramente insuficiente y presentamos

enmiendas parciales para tratar de mejorarla participamos en todas las ponencias habidas quisimos debatir punto por punto

en ese proyecto creo que es obligación de los grupos hacer ese ejercicio de responsabilidad política y a pesar de que pudiéramos no estar de acuerdo

no se podía basar únicamente en decir que era un proyecto de ley insuficiente y presentar la correspondiente enmienda de totalidad sino además de eso presentar enmiendas parciales un buen número de enmiendas parciales y no solo eso sino además defenderlas tanto en la ponencia que se constituyó como en la comisión correspondiente

y poder tener la mejor ley de transparencia nacional finalmente a pesar de que se pudieron introducir algunas medidas planteadas por upyd

de ahí el voto en contra de upyd a esa ley de transparencia

creo que es bastante evidente que esta ley de transparencia nacional que ha día de hoy tenemos es claramente insuficiente no cumple los parámetros

como un derecho fundamental y además no recoge tampoco sanciones y ni siquiera ha sido finalmente una ley orgánica

fundamental y además ha sido una ley que se ha tramitado de manera opaca en fin

a todo ese proceso y al contenido también de esa ley de transparencia nacional que evidentemente supone un paso respecto a lo que teníamos que era nada pero que en todo caso queda lejos de lo que nosotros queríamos tener creo que

deberá corregirse en el futuro deberá mejorarse para sobre todo pueda recogerse que el derecho a la información de los ciudadanos pueda ser considerado como un derecho fundamental ya digo que esta ley de transparencia nacional es claramente

y habrá que modificarla en los próximos tiempos nosotros en todo caso lo plantearemos en el congreso de los diputados también es cierto que no basta

aprobar una ley de transparencia nacional o autonómica para que haya transparencia creo que lo más importante de todo más allá de la aprobación de leyes

transparente que creo que es lo que ha faltado por parte de los partidos políticos y de las instituciones españolas

ha habido muy poca transparencia y eso ha tenido resultados ciertamente negativos ha habido un proceso de alejamiento por parte de los ciudadanos de los

de los sindicatos o de las asociaciones empresariales al observar que en españa efectivamente no había la suficiente transparencia sino que reinaba sobre todo

esto deberá cambiarse en los próximos años la transparencia es absolutamente fundamental para devolver la confianza a los ciudadanos ya digo y decía

la actitud de los representantes políticos la actitud de los partidos políticos para que lleguen a comprender que la información que poseen las instituciones

únicamente de las instituciones sino que es una información que es de los ciudadanos y que por lo tanto los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a exigir esa información y las instituciones y las distintas instituciones tienen la obligación de entregar esa información al conjunto de los ciudadanos es decir

a los ciudadanos la información es de los ciudadanos y ya decía que hay que cambiar actitudes sin ir más lejos no haría falta

por ejemplo que obligue a los partidos políticos a publicar sus cuentas anuales en sus correspondientes páginas web sin embargo lo cierto es que a día de hoy únicamente

y lo ha venido reclamando al resto de partidos políticos para que ellos también hagan lo mismo en principio no haría falta ningún tipo de ley para que los partidos políticos sin ir más lejos publicaran sus cuentas en sus correspondientes webs no se ha hecho así y esto también ha generado desconfianza

de aprobar leyes no se trata solo de perfeccionar las leyes existentes de mejorarlas sino que sobre todo lo que hay que cambiar en el conjunto de españa sobre todo es la actitud de los representantes institucionales e incluso también la actitud de los propios ciudadanos creo yo

exigentes en todo lo relacionado con la transparencia y la recepción de los datos que insisto son suyos los datos que tienen

los ciudadanos deberían ser más exigentes más exigentes para exigir todo esto al conjunto de las instituciones y de los partidos políticos en los últimos tiempos ha habido demasiada opacidad en españa ha habido demasiado despilfarro de dinero público en españa ha habido demasiada corrupción y corrupción política todo esto todo esto se podía haber evitado no solamente con una ley de transparencia nacional digna de ese nombre sino sobre todo con la actitud de los representantes políticos con la actitud de los partidos políticos de ser mucho más transparentes

lo han sido en los últimos tiempos en españa en los últimos tiempos en las últimas décadas ha reinado la opacidad ha reinado el derroche del dinero público y ha reinado la corrupción y todo esto

digamos que la ley de transparencia es un paso más que debería cambiar todo este estado de cosas se tiene que entender que los ciudadanos tienen todo

con el dinero público qué es lo que se hace con el dinero que aportan a las arcas del estado o a las arcas de la comunidad autónoma vasca tienen todo el derecho del mundo

del último euro que utilizan las diferentes instituciones y creo que hay mucho por andar

por recorrer tanto en el conjunto de españa como también en euskadi por lo tanto puesto que no hemos conseguido tener ni mucho menos la mejor ley de transparencia nacional

al menos queremos que euskadi pueda tener su propia ley de transparencia que incluso pueda o pudiera corregir o completar lo que la ley de transparencia nacional no hace en ese sentido va nuestra proposición no de ley una proposición no de ley como han visto todos ustedes

una de las iniciativas más extensas que se han planteado en el parlamento al menos

con mucho contenido y muy exigente y finalmente hemos firmado una transaccional con el resto de grupos una transaccional que nosotros consideramos puede ser considerada una transaccional de mínimos que no recoge ni de lejos todo lo que a nosotros nos hubiera gustado pero que en todo caso puede ser un paso para plantear la necesidad de tener

sino una ley de administraciones públicas

en esta proposición no de ley se tendría que haber hecho mucho antes se tendría que haber hecho mucho antes pero en todo caso nunca es tarde ya digo que hemos firmado una transaccional que nosotros podríamos entender como una transaccional de mínimos si nosotros tuviéramos en este parlamento mayoría absoluta no habríamos firmado esta transaccional pero teniendo en cuenta que tenemos un solo diputado

firmado entendiendo ya digo que es un paso en la buena dirección cuando llegue el proyecto de ley del gobierno y espero que llegue cuanto antes antes en todo caso del treinta de junio

de presentar todas las enmiendas que sean necesarias y en nuestro caso al menos puedan incorporarse todos estos principios que nosotros hemos incluido en esta

el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona el derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas a todas ellas

que realicen funciones públicos y o reciban dinero público a todas ellas

el derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada recibida o en posesión de las entidades públicas sin importar cómo esté almacenada realizar solicitudes debe ser sencillo rápido y gratuito no un camino tortuoso o prácticamente imposible de transitar

tiene que ser de un modo sencillo rápido los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes principio de publicidad de la información el secreto y la denegación de la información son la excepción las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas cosa que a día de hoy no ocurre

o la no contestación a las solicitudes realizadas las entidades públicas a iniciativa propia deben poner a disposición del público información básica y esencial y esto también es importante sin que sea necesario realizar incluso una solicitud

deben poner a disposición del público esa información el derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente el gobierno

de ese derecho y se establecerán en la ley sanciones en relación a las infracciones que se cometan sobre lo especificado en el texto legislativo proponíamos también iniciativa instar al gobierno al desarrollo de un portal de transparencia se llame como se llame que incorpore en todo caso una serie de datos que nosotros hemos incluido

las retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio de los cargos electos altos cargos y miembros del gobierno el registro de actividades bienes e intereses de los cargos electos

la totalidad de la contratación de la administración pública vasca las listas de contratación temporal del personal

por el consejo de gobierno las concesiones administrativas los convenios de colaboración y el régimen subvencional de la administración del gobierno el inventario actualizado de los procedimientos administrativos las resoluciones administrativas y judiciales

y el gasto público realizado en campañas institucionales y sus destinatarios es posible que parte de esto ya se haga ciertamente en los últimos tiempos ha habido un avance y seguramente parte de esto ya se hace pero hay mucho camino que recorrer

se incluyera un registro de contratos un registro de adjudicatarios

con el conjunto de los suscritos en el ámbito de la administración autonómica para su recopilación y consulta y un registro de subvenciones con todas aquellas concedidas en el ámbito de la administración autonómica en definitiva una iniciativa ambiciosa

trataba de recoger esos principios que nosotros consideramos esenciales y que el proyecto de ley del gobierno debería incluir efectivamente esperamos que este proyecto se presente cuanto antes no queremos prejuzgarlo tampoco trabajaremos sobre él presentaremos las enmiendas que consideremos y trataremos de mejorarlo en todo caso por lo demás solamente me queda agradecer a los grupos políticos que han firmado esta transaccional y que votaran a favor de la iniciativa

en cervantino somos representantes no somos sustitutos por lo tanto representamos a la ciudadanía no la sustituimos el derecho a decidir está en la ciudadanía la ciudadanía

es el sujeto político la que tiene que marcar la política si no tenemos ese concepto

que se hacen continuamente y que alejan cada vez más la ciudadanía

de la gente que nos dedicamos a la política a veces realmente

cómo se dice una cosa cómo se hace otra cómo se justifican decisiones por conceptos cuantitativos dejando de lado la coherencia

la información no es una materia pasiva la información es una materia dinámica y la información es creadora de opinión

la información es un elemento que no solo hay que poner íntegramente

sino que es la propia ciudadanía la que tiene que tener capacidad de incidir en qué tipo de información es a la que puede tener acceso

entendemos una ciudadanía que tiene que tomar decisiones y para tomar decisiones es fundamental tener información previa la información no es un elemento supletorio decorativo

es el eje para poder tomar decisiones con responsabilidad

muchas veces vemos que aquí se está racaneando

se está haciendo un ejercicio de mangoneo de información que le tiene que corresponder a la propia ciudadanía entendemos

como un ejercicio de honradez democrática no solo dar información sino crear canales crear elementos crear lugares de participación ciudadana

sino que se crea donde la información sea algo compartido porque se es partícipe de ese ejercicio político

nos asombra que partidos que hacen un discurso a favor de la transparencia

digan aquí hoy que la comunidad autónoma vasca no necesita una ley de transparencia eta hori da gertatuko dena gaur hemen

buenos días a todos la exigencia de los ciudadanos hoy ante la política

el qué se hace que es muy relevante es muy importante también lo es el cómo se hace y esa exigencia es una exigencia cada vez más compartida ya no importa saber qué gestiones se hacen para resolver los problemas

cómo se hace esa gestión cómo se hace y qué políticas se llevan a cabo

y cómo se comportan quienes hacen esas políticas por tanto la necesidad de hablar de transparencia hoy ya no es una cuestión menor es una cuestión absolutamente vital porque los ciudadanos han decidido

en sus administraciones y en los cargos públicos que las dirigen hace falta tener credibilidad y hoy la transparencia es un valor

qué se hace cómo se hace quién lo hace y cómo se comporta el que lo hace esas cuestiones son cuestiones que deben abordarse deben tratarse

que diferentes administraciones que diferentes partidos políticos en diferentes ámbitos ya están impulsando quiero poner como referencia un acuerdo importante entre partidos políticos vascos importante en el ámbito de la administración local a nivel

eudel un acuerdo amplio entre el partido popular el partido nacionalista vasco y el partido socialista en eudel para impulsar ese valor de la transparencia

locales vascas en todos los ayuntamientos de euskadi

están siendo pioneras en la defensa de estos valores y es una cuestión importante que también la administración en todos los ámbitos vaya asumiendo

filosofía qué se hace cómo se hace y en ese sentido hay muchas preguntas ciudadanas que afectan precisamente a ese concepto de la transparencia que no deja de ser otra cosa que también el concepto como decía antes de la credibilidad nuestro grupo

que pueda ser un debate lo más amplio posible como lo ha sido ya en otros ámbitos de la administración vasca como he dicho anteriormente especialmente la administración local

que existe entre los partidos se pueda extender también en este parlamento vasco para tener una ley de transparencia referente de lo que debe ser y cómo debe actuar nuestra administración autonómica en el texto que se ha transado

algunos contenidos de mínimos pero a mí me gustaría hacer hincapié en que falta uno

básicos que consideramos pilares de mínimos que deben dotar cualquier ley de transparencia son muchísimas cosas y afectan a muchísimos ámbitos

ciudadana y que deben resolverse en esa ley cuando sea presentada

en la transacción que se ha producido se deben hacer públicos todos los contratos y convenios que firma la administración el ciudadano debe de saber y debe conocer qué es lo que hace su administración con quién lo hace con quién contrata por qué contrata cuáles son los requisitos cuáles son los criterios de adjudicación

tanto en el ámbito de la contratación como el de los propios convenios primero de los pilares y esto se recoge en la transacción que hemos firmado los grupos políticos

segundo de los pilares especialmente en un momento de dificultad económica de estrecheces económicas es necesario hacer públicos también

de las partidas de los criterios y de las adjudicaciones o de las personas y entidades

beneficiadas por una subvención pública se debe dar conocimiento de todo esto se debe decir quién ha obtenido una subvención qué persona ha obtenido una subvención

por qué lo ha hecho cuáles son los criterios para que ese dinero público se distribuya de esa manera y cuáles son por supuesto la lista de beneficiarios pero

proposición no de ley y que nosotros lo digo desde ahora y quiero anunciarlo en este momento

de esto una cuestión importante la transparencia también a los gestores que realizan las diferentes medidas en la administración pública en eudel y los ayuntamientos

que se conozca cuál es el patrimonio de los gestores que están realizando esa acción pública en cada una de las administraciones

lo quiero decir como digo en este momento me parece un asunto muy importante que no se ha incluido en este texto nuestro grupo va a solicitar que la ley de transparencia

los patrimonios desde el lehendakari hasta el último de los consejeros y también de todos y cada uno de los setenta y cinco parlamentarios vascos la transparencia es también mostrar exactamente

que están al cabo de la administración pública la transparencia empieza por uno mismo y la transparencia debe seguir también ese criterio para ser creíble lo primero que tiene que hacer un representante público es mostrar

lo aplica a su propia persona en lo que tiene que ver con el ámbito profesional por tanto insisto en este asunto está muy bien como se ha hecho también en la administración local hacer públicos contratos y subvenciones pero una exigencia que los ciudadanos vascos puedan saber y no entiendo por qué no lo pueden hacer todavía cuál es el patrimonio del señor lehendakari

del resto de miembros del gobierno vasco o de parlamentarios de esta cámara creo que eso también es transparencia creo que lo están haciendo muchos ayuntamientos en un acuerdo de amplio espectro político en el ámbito de eudel y no veo razón alguna

sean ajenos a esa decisión en el ámbito de las elecciones señora mintegi simplemente una reflexión

me gustaría si tiene a bien que en este concepto de la transparencia entendida como uno mismo porque no me negará que los ciudadanos hoy hacen de esto una exigencia

es una exigencia ciudadana me gustaría saber en esto de las elecciones que usted también ha planteado

si cuando su grupo tiene la oportunidad de hacerlo lo hace me gustaría conocer y no lo sé si esto es así creo que no si hay algún solo cargo público de bildu que haya hecho público su patrimonio si alguien

y sobre todo y especialmente en el ámbito de la diputación de gipuzkoa también si es así si es así seguramente estaremos más cerca de entendernos en un ámbito que es fundamental

en el qué se hace en el cómo se hace y en el quiénes también lo hacen como digo nosotros nuestro grupo va a votar a favor de que esta ley de transparencia se pueda iniciar lo antes posible creo que está en el calendario de la previsión del gobierno

y hacerlo con el rigor necesario un nivel de exigencia que corresponde a lo que los ciudadanos exigen y es también este asunto como digo un asunto relevante

natural y es razonable lo han hecho otros antes que nosotros y especialmente la administración local vasca lleva tiempo haciéndolo precisamente

municipal pero lo incluyo también han considerado que es necesario hacer esto

pero no olvidarse ninguno de los tres pilares que afectan

los patrimonios de los gestores son hoy una obligación a incluir

no se ha incluido no se ha introducido en esta pnl

hay tiempo para recorrerlo hay tiempo para estudiarlo hay tiempo para escuchar y observar la propuesta del gobierno y después

me parece que es un asunto que no es menor queríamos dejarlo claro desde el minuto uno

inguruko gai guztiak batera landuko dituen legea den decía en euskera que en mi intervención de hoy quiero compartir con ustedes los argumentos

regular las cuestiones relativas a la transparencia no de forma aislada sino de forma conjunta con las normas que disciplinen la participación ciudadana

la forma de organización de la administración y de las empresas del sector público en el seno de la ley que regule todas las cuestiones nucleares sobre la organización y funcionamiento de nuestra administración

una transparencia para algo y sobre algo tiene que ver con todas estas cuestiones a ver si consigo explicarme y de paso convencerles sobre todo mintegui andreari esatea lasai

régimen y funcionamiento de nuestras instituciones de autogobierno así como las normas de procedimiento administrativo que deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del país vasco y hemos regulado mucho sobre nuestra autoorganización

muy dispersa e incompleta regulando algunos aspectos sí y otros no en función de las necesidades puntuales y apoyándonos a menudo en la legislación básica para completar lagunas han transcurrido casi treinta años desde que se

de la administración vasca con la ley de gobierno esa ley reguló

pero no tenemos una ley que regule de forma conjunta el funcionamiento de la base y ciertamente tras treinta años los cambios sociales legislativos

que hemos experimentado desde entonces hacen inaplazable una actualización de la normativa que regule la organización y sobre todo en lo que ahora nos interesa

de nuestra administración vivimos en sociedades complejas en las que la necesidad de adaptación exige procedimientos cada vez más abiertos

necesitamos establecer mecanismos permanentes de diálogo negociación y acuerdo con la ciudadanía sobre las decisiones más importantes que les atañen directamente

cercano y dialogante estamos apostando por un gobierno abierto a la participación de la ciudadanía y para eso sirve la transparencia para hacer

porque si queremos fomentar la participación tenemos que fomentar una participación informada yo no me explico una participación

no conozcan de lo que están opinando lo mismo que ocurre en un contrato privado no admitiríamos que nos obligaran a firmar un contrato con cláusulas

porque las entenderíamos anulables y en consecuencia una participación que no sea informada es una participación que tiene una funcionalidad nula por lo tanto si queremos impulsar el gobierno abierto basado en la transparencia y en la participación tendremos que regularlas conjuntamente

en un contexto de transparencia necesitaremos tener esos datos objetivos necesitaremos ser transparentes con nosotros mismos

que lo que no se evalúa no mejora por lo tanto estaremos obligados a evaluar nuestros programas nuestros planes y el impacto de nuestras leyes

pueda tener los datos y conocer sobre los que va a opinar y de esta manera para que opine y decida con argumentos a su vez tener que llevar acabo la evaluación de nuestras políticas públicas nos lleva a tener que planificar con indicadores y objetivos sobre los que poder hacer evaluación porque si desconocemos los objetivos que tenemos que cumplir no se podrá evaluar su cumplimiento y no se nos podrán exigir responsabilidades

la administración deberá organizarse de una forma transparente

ordenando su participación en sociedades públicas y clarificando la composición del sector público al que esas responsabilidades también

si queremos impulsar y hacer de la nuestra una administración participativa transparente que evalúe y planifique sus políticas públicas y un gobierno responsable los aspectos relacionados con estos principios deben

en una misma ley que sea la columna vertebral sobre la que se articule la organización y el funcionamiento de nuestra administración esto no puede hacerse mediante una ley de transparencia que pretenda regular de forma y de espaldas a esas cuestiones al señor maneiro le diría que en toda su exposición de motivos viene a avalar y a reconocer estas tesis y por lo tanto es coherente que hayamos firmado finalmente la enmienda

una ley de transparencia pero hablaba de participación ciudadana de la evaluación pública de las acciones de las administraciones

de las tecnologías de la información de la red de empresas y entidades eta nik esango nuke mintegi andreari gauza berbera gertatu

a veces de tanto repetir una palabra como en este caso repetimos la palabra transparencia queda más patente que nunca que no sé si todos buscamos el mismo objetivo desde luego los socialistas creemos y lo creímos en la legislatura pasada que se hacía necesario realizar un nuevo contrato

donde una ciudadanía de manera corresponsable pudiera participar en la gestión de lo público y también para que las políticas públicas pudieran evaluarse y para que este paso

fueran accesibles transparentes y que estuvieran en permanente escucha activa de lo que estaba pasando es decir lo que se requería y lo que yo creo que se sigue requiriendo es que cambie de manera sustancial la cultura interna de las administraciones públicas y de los responsables políticos de esta creencia surgió en la legislatura pasada

fueron unos primeros pasos a los que se sumaron otros muchos en otras comunidades autónomas y ahora nos toca legislar en esta comunidad autónoma el gobierno se ha comprometido a traer al parlamento una ley que contemple el derecho a la información

de gobierno abierto y de open data y desde mi grupo la posición que tenemos es esperar a esa ley que entre en el parlamento y desde ese punto de vista

no es tan importante el adjetivo como lo sustantivo y lo sustantivo aquí de lo que se trata es de que el gobierno ha elegido una técnica legislativa si yo hubiera estado en el gobierno hubiera elegido otra pero es igualmente respetable por lo tanto

se desmerece en absoluto el objetivo de conseguir el acceso de la ciudadanía a la información la transparencia activa la transparencia pasiva y todo lo que ello conlleva que es yo creo que lo que tiene que ser el objetivo fundamental de nuestra tarea

visitar con informaciones sobre la comunidad autónoma por ejemplo las indemnizaciones que mencionaba el señor maneiro pues están con informaciones también en formato reutilizable que eso es muy importante y yo agradezco también

hecho mención al formato reutilizable porque no es solo la remisión sino que la ciudadanía pueda reutilizar y darles un valor añadido a esas informaciones asimismo se creó el perfil del contratante el registro de empresas adjudicatarias enfin se dieron esos pasos que ahora tienen que verse consolidados de manera normativa para que se consoliden y es cierto que si comparamos nuestro país

hace nada menos que doscientos años la verdad es que tampoco ha cambiado tanto la cuestión porque se puede resumir en la misma frase la ciudadanía tiene derecho

a saber cómo se utilizan sus recursos y a saber en qué se gasta hasta el último euro y si este sirve para el bienestar colectivo

política y la transparencia es una condición previa imprescindible para que podamos ejercer gran parte de nuestros derechos fundamentales y también yo creo que la transparencia además de otras medidas lógicamente es una de las mejores vacunas

además para tejer complicidades con la ciudadanía para situar sus preocupaciones en el centro de la agenda pública tenemos que dejar también los políticos esa zona tan de confort que habitábamos hasta ahora y entrar ha adaptarnos a las reglas de la nueva era

sobre más temas que nos incumben y el gobierno abierto permite integrar en esa gestión pública las propuestas individuales convirtiendo así en inteligencia colectiva porque hay mucha riqueza en la administración y hay mucha riqueza en la ciudadanía

la transparencia hacía dentro y hacía fuera hacía dentro con nuestros propios funcionarios que tienen muchísimo conocimiento de la administración y que pueden aportar mucho y que además de lo que se trata es de que la administración cuente con ellos y colabore con ellos a la hora de funcionar y transparencia hacía fuera hacía los ciudadanos

puedan participar en aquellas cuestiones que consideren de interés y puedan enriquecernos de esa manera al mismo tiempo también creo que lo mencionaba la señora otadui se da la evaluación de las políticas pública claro ante ese sometimiento continuo constantemente veremos evaluadas si son realmente efectivas si cumplen para el objeto para el que fueron creadas

la transparencia puede ser activa y puede ser pasiva la administración

al constituir el derecho a la información del ciudadano con la ley que hagamos estamos haciendo una transparencia pasiva es decir

pero también en euskadi hemos dado pasos pioneros que se continúan dando en estos momentos y que esperamos verlos consolidados en la futura ley que es la transparencia activa es decir

eso es el open data y ahí es donde entra un aspecto que tenía usted en su enmienda

si todas las administraciones tuvieran open data además de los convenios de colaboración inter administrativa y de interoperabilidad entre administraciones

porque las otras administraciones podrían utilizarlos para dar un mejor servicio a la ciudadanía por lo tanto hay muchas cosas que están

yo creo que con la aprobación de la ley de transparencia en españa y la futura ley de transparencia en euskadi daremos un paso de gigante yo creo que además hay que continuar haciendo esfuerzos en otros temas

el procurar que nuestros ciudadanos cuando reciben una carta de que han recibido una subvención o les ha sorteado un piso y les ha tocado que sean capaces de entenderlo y de no pensar justo que le ha pasado lo contrario que es que no les ha tocado o no han recibido la subvención porque no entienden

o también el proceso en el que entró en la legislatura pasada la administración vasca que es el repensar los procesos para hacerlos más sencillos

redunda en una riqueza para la propia administración y un ahorra también para los de fuera creo recordar que con el tema de la interoperabilidad y el que

no tengan que aportar aquella documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas según

estatales estábamos generando en euskadi un ahorro de ochocientos millónes de euros en el sector privado yo creo que en los tiempos que corren en cualquier tiempo es importante la cuantía

por lo tanto yo creo que transparencia participación de la ciudadanía y colaboración entre los ciudadanos y la administración y entre administraciones públicas

trabajando buscando las soluciones o las respuestas a las mismas preguntas tendremos que colaborar más y acercarnos más que marcar las diferencias por lo tanto yo creo que la enmienda que hemos

la necesidad de legislar la transparencia marca al gobierno también señala el camino de que la necesidad de que el portal de transparencia sea actualizado por lo menos con una diligencia anual en formato preferentemente reutilizable porque sino al final simplemente te remite a unos enlaces que no pueden ser reutilizados ni general ningún valor añadido

suma unas propuestas que hacía el señor maneiro en su iniciativa original que consideramos que completan bastante lo que ahora mismo está en el portal de transparencia que es el que aparezcan los convenios que firma la administración que no los contratos que ya están

y las subvenciones otorgadas por la misma yo la verdad es que me congratulo de que esta proposición no de ley sea aprobada por esta mayoría de la cámara haya sido apoyada por la mayoría de los grupos de esta cámara creo que es un buen precedente para el debate que tendremos próximo semestre cuando la ley entre en el parlamento porque creo que tenemos que convencer a la ciudadanía con hechos

a esa ciudadanía que se ha alejado de la política de que la política sigue siendo una herramienta eficaz para ellos y que nosotros estamos dispuestos a poner esas herramientas
en sus manos nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia

era interesante tener una ley de transparencia específica y así lo hemos defendido siempre

somos nosotros capaces de escuchar los argumentos del resto de partidos políticos y del propio gobierno

casi nos da hasta igual que esta ley de transparencia se pueda llamarle ley de trasparencia o de otro modo lo importante es el contenido

bastaría con observar el contenido de nuestra proposición no de ley qué es exactamente lo que proponemos

por ejemplo sin ir más lejos con la enmienda del señor maroto o con la enmienda de la señora mintegi pero si ustedes han enmendado el contenido que nosotros proponíamos fíjese usted señor maroto en nuestra iniciativa de doce páginas con todo lo que proponíamos en esa iniciativa y resulta que usted

para borrar todo lo que se proponía y únicamente instar al gobierno vasco a que presente una ley de transparencia en el plazo de seis meses hombre señor maroto y encima baja usted aquí a la tribuna intentando dar lecciones al resto

y acusándonos de que en esa enmienda transaccional nosotros no hemos incorporado asuntos que usted considera importantes pero que no ha planteado a través de su enmienda de totalidad al revés

con su enmienda de totalidad todos los objetivos que nosotros habíamos planteado y pretende dar lecciones al resto y decirnos que esta enmienda de transacción es insuficiente y se queda corta desde luego esta enmienda de transacción se queda corta en relación a lo que upyd proponía para eso no hace falta más que saber leer y haber leído nuestra propuesta original es una enmienda de transacción

que va más allá en todo caso de lo que proponía la enmienda de totalidad de la señora mintegi a la que únicamente le importa el nombre y se presenta aquí como

ley de transparencia pero no le importa el contenido lo importante es el contenido y creo que hemos sido coherentes y vamos a ser coherentes

este proyecto de ley que va a presentar el gobierno efectivamente recoja todos los principios que nosotros planteábamos en esta iniciativa original y que ustedes han para reducirla para rebajarla a usted únicamente le importa el nombre a nosotros nos importa el contenido lean ustedes nuestra iniciativa original y todo lo que proponíamos en ella

ya digo a usted técnicamente le aparece el nombre y el señor maroto del patrimonio de los parlamentarios que efectivamente también debería estar señalado en este proyecto de ley que presente el gobierno vasco pero si lo proponíamos nosotros en nuestra iniciativa original y usted lo ha enmendado para quitarlo señor maroto eso que usted proponía está incluido en nuestra iniciativa

ha presentado una enmienda de totalidad efectivamente esta enmienda de transacción se queda corta en relación a lo que nosotros proponíamos no hay más que leer los textos que han presentado los distintos

tengo aquí el índice de transparencia de las diputaciones objetivos y características básicas un estudio realizado por transparencia internacional españa diputación

transparencia global noventa y siete coma cinco sobre cien no gobierna

pero si vemos la puntuación que recibe la diputación provincial de gipuzkoa

cincuenta y dos coma cinco la menos transparente la que gobierna el pp qué cosas el partido popular

cuyo gobierno es el más opaco de la historia de la democracia el partido político de bárcenas

y usted está preocupado de que los parlamentarios publiquemos o se publique el patrimonio

lo que tenemos bueno en mi caso al menos ya lo hago a través de la web de upyd y en todo caso estaba recogido en la iniciativa original que usted ha enmendado

es el contenido y estaremos muy atentos a lo que el gobierno traiga y a ese proyecto de ley que traiga el gobierno nos importa el contenido no tanto el nombre si en ese proyecto se recogen los principios y las ideas fundamentales que nosotros proponemos

si no presentaremos la correspondiente enmienda de totalidad o todas las enmiendas parciales que sean necesarias para mejorarlo pero creo que ha sido un buen acuerdo

intentado obligar al gobierno a realizar una serie de cosas desde luego esta transaccional queda muy lejos de lo que nosotros queríamos evidentemente pero es algo más en todo caso que lo que proponía la enmienda de totalidad

le importa el nombre pero no el contenido de la ley

viajes y los gastos de los parlamentarios de esta cámara nosotros hemos pedido en varias ocasiones que se nos traslade esa información
amaitzen joan maneiro jauna para que los ciudadanos puedan saber

los viajes y los gastos en los que incurren los parlamentarios vascos se nos denegó la pasada legislatura la presidencia de la mesa no era de upyd precisamente se nos negó permanentemente y es evidente también una gran opacidad

hay mucho que hacer importará el contenido esperamos que el gobierno vasco presente este proyecto cuanto antes y que podamos trabajarlo

no basta con hablar hay que actuar podemos observar qué es lo que cada partido político ha hecho allí donde ha gobernado

podemos observar y comparar qué es lo que exactamente se ha hecho y no se ha hecho amaitzen joan
en todo caso nuestro objetivo es que este proyecto llegue cuanto antes

y pueda cumplir todos esos principios recogidos en las doce páginas
de la proposición no de ley planteada por upyd amaitzen joan gracias eskerrik asko maneiro jauna

legebiltzarkideak egun on para contestar al señor maroto hace poco una parlamentaria de mi grupo me decía

ha dado cuenta de su patrimonio cinco veces porque cada vez que entraba en una institución y salíade ella

patrimonio y lo ha hecho en un ayuntamiento en una diputación y en este parlamento y cuando salga de él volverá dar por sexta vez parte del patrimonio que posee lo que me extraña es que ustedes no lo hayan hecho porque los veintiuno parlamentarios de este

ya habían dado parte de su patrimonio al inicio de esta legislatura por lo tanto
me choca que me haga esa pregunta isiltasuna mesedez

ni de contenido es mucho más profundo todavía es cuestión de actitud ikusten ari naiz hemen eta

porque no buscamos el mismo objetivo todas las personas eta espero dut literal izatea el mismo objetivo todas las personas que están hablando aquí de transparencia

herritarrena da erabakiak hartzeko eskubidea la ciudadanía no está enajenada de su capacidad de tomar decisiones es a la ciudadanía a la que le corresponde tomar decisiones y sus representantes políticas y políticos

hacer una gestión en base a un proyecto que ha sido refrendado en un proceso electoral y aquel proyecto que ha conseguido mayor apoyo electoral es aquel que se lleva a la práctica

porque esa es la decisión que ha tomado la mayoría de la ciudadanía eta hemen

sino qué actitud se tiene respecto al papel que corresponde a la representación política respecto a la ciudadanía y desde luego

de técnica jurídica están desvirtuando exactamente

que es mucho más que poner una página web y abrir un buzón o tener una open data para cruzar datos de las informaciones que se ponen en red es bastante más que eso es toda una conceptualización de lo que es

de lo que es la actividad política es bastante más que eso y eso es lo que están haciendo que aquí se están escudando en una

técnicas para evitar precisamente algo que tiene que ir al fondo de la cuestión y es cuál es

cuál es nuestro trabajo respecto al trabajo político que nos corresponde

claro en la exposición de los motivos que nos llevan a apoyar esta iniciativa entre otros que el momento para detallar cuáles son los contenidos y las acciones que debe llevar a cabo esa ley de transparencia será el momento en el que el gobierno presente

forzar al gobierno a que cumpla con lo que dice que va a hacer por eso hemos presentado

ya que hemos entrado en la palabra mágica que es la de los contenidos lo que he detallado es los tres pilares que a mi juicio

cuando se gobierna y este parlamento y este gobierno vasco tienen una asignatura pendiente por tanto son tres pilares

y yo he hecho referencia a un asunto que es prioritario también para muchos ciudadanos por tanto contratos y convenios

también los convenios las subvenciones y digo cuál es la razón para que un ciudadano vasco no conozca cuál es el patrimonio del lehendakari o de la señora mintegi que después hablaré de ella me ha dejado sorprendido con su respuesta

o cualquier otro parlamentario de esta cámara o de usted no pero no yendo a la página web de upyd que no sé cómo lo pone porque no tiene muchas visitas sino

es fundamental conocer ese extremo y no sé la razón por la que le ha puesto tan nervioso señor maneiro que hagamos esta reflexión desde el grupo popular en el parlamento vasco

que efectivamente en una ley de transparencia habrá que atender las cuestiones que son prioritarias para los ciudadanos vascos y en el ámbito de la transparencia que no es otra cosa que la coherencia y también la credibilidad hay que hacer esas tres cosas las tres cosas bien como veo que le gusta poner ejemplos señor maneiro y como veo que es recurrente la necesidad de poner ejemplos

si quiere un ejemplo de alguna administración vasca que haya hecho precisamente cumplimiento de los tres pilares no solo de dos no solo contratos y convenios y subvenciones también de patrimonio de sus integrantes le he referido al acuerdo de eudel

se ha pedido a los ayuntamientos vascos que hagan eso el primero que lo ha hecho es un ayuntamiento del partido popular quiere que le diga cuál está aquí en álava quiere que le diga cuál

ponga si quiere un ejemplo de lo que se ha hecho en materia de transparencia utilizando a un ayuntamiento del partido popular aquí el de vitoria donde está la sede del parlamento y he dejado claro también que es una obligación

los gobernantes y de los legislativos también pero también de los ejecutivos hoy ser eficaz en el qué se hace pero absolutamente con la misma intensidad en este momento el cómo se hace y el quiénes o cómo son los que lo hacen yo

desconozco como digo la razón por la que usted se ha puesto tan nervioso con este asunto lo que sí quiero decir es que

creo en el lenguaje corporal y cuando yo le preguntaba si algún cargo público de bildu ha hecho público su patrimonio veía a la señora mintegi hacerme así con los dedos que quería hacer algo así como cientos

la diferencia entre dar cuenta del patrimonio

igual que el resto de los parlamentarios de esta cámara por obligación legal en un sobre cerradito que se ha depositado

su patrimonio está en un sobre cerradito en el parlamento y decir y hacer público ese patrimonio para que todos los ciudadanos puedan saber cuál era el patrimonio

este parlamento es muy diferente es radicalmente diferente

de ese extremo porque eso usted que predica las exigencias ciudadanas eso hoy se ha convertido en una exigencia ciudadana es verdad

y tertulias sin duda alguna pero es una exigencia ciudadana que no me ha quedado claro si bildu comparte o no

es diferente que todos los concejales de bildu o cualquier otro partido presenten y den cuenta en un sobre cerrado en su registro cuál es el patrimonio para que los letrados lo puedan comprobar que dar cuenta supongo que habrá alguno

por lo demás como decía esperaremos que ese trámite legislativo se lleve a cabo

aspectos que deben ser regulados me parecía fundamental

y a esos tres pilares básicos nos remitiremos y lo hará nuestro grupo cuando se presente esa ley

porque espero que todos ustedes entiendan que son fundamentales señor maneiro en esa ocasión habrá que hacer lo mismo que se dice
algunos lo pueden hacer porque gobiernan otros no muchas gracias eskerrik asko maroto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

verdaderamente lamento señora mintegi el enfado que

en esta cámara porque yo la verdad es que también cuando decía que buscábamos cosas diferentes es que me había costado entenderle a usted realmente qué es lo que

o por lo que tiene que tener de contenido una futura ley de transparencia en euskadi porque

directa y yo creo que primero estamos en una democracia representativa pero es verdad que los tiempos han cambiado

el adaptarnos a esa nueva era que ya se ha iniciado luego entonces mejoremos la democracia que tenemos porque además tenemos está claro

y hagamos que esa democracia sea mucho más participativa pero ojo sin que los políticos o los responsables políticos renuncien a sus responsabilidades

en la participación ciudadana para no tomar las decisiones que se tienen que tomar en cada momento yo creo que tienen que ser piezas

pero para que nuestras políticas sean mejores es decir que ellos nos enriquezcan

que los ciudadanos enriquezcan a los gobiernos que sea un juego entre todos pero con ese objetivo mejorar la democracia mejorar la calidad de la democracia tiene que ser así es que yo sino de verdad señora mintegi sé que además usted hace el debate desde la más profunda honestidad pero realmente

opuestas y luego además creo que tampoco

decía usted es que esto es un buzón que abren generosamente las administraciones no a ver

que es totalmente diferente el concepto no es un buzón no es una página web es algo más es mucho más es primero un portal físicamente le podemos decir portal o página web pero donde las personas participan es decir el gobierno si quiere cuelga una iniciativa en nuestra época por ejemplo en la legislatura pasada donde se hizo la mayor participación de la historia fue en el proyecto de ley de vivienda por qué bueno pues porque a la ciudadanía yo creo que es un tema que le preocupa mucho y hubo una participación increíble

recogimos muchísimas cosas en el proyecto de ley y yo le voy a poner un ejemplo de mi departamento con el decreto de víctimas de abusos policiales lo colgamos también en irekia y recibimos muchas opiniones críticas también pero todas ellas sumaron para que el proyecto fuera mejor para aportarnos a nosotros en aquel momento por lo tanto yo no despreciaría yo no diría es que es una página web y un simple buzón no no es que es mucho más

y debe de servir al gobierno y debe de servir a los ciudadanos por lo tanto yo creo que tenemos que seguir caminando en esa línea entonces cuando venga la ley de transparencia al parlamento pues bueno ya veremos se incluirá lo que sugiere el señor maroto muchas de las cuestiones que el señor maneiro proponía en su proposición no de ley

se pueden hacer como era incluir las subvenciones que yo creo que es un apartado importante incluir los convenios bueno pues cuanta más información esté en manos de la ciudadanía

es otro tema que es muy interesante porque genera valor añadido es decir hay personas que están en la sociedad que generan páginas web o servicios

de los datos que la administración pone a disposición de ellos y al final es devolver la riqueza de los ciudadanos que hemos utilizado las administraciones con sus impuestos es decir

a veces valor añadido sin tener un valor económico detrás y otras veces con valor económico pero los ciudadanos todo eso es transparencia todo eso son conceptos nuevos

para perfeccionar la democracia representativa que tenemos y que está claro que los ciudadanos a día de hoy a parte de que han cambiado mucho pues no les satisface completamente

cuando al ley llegue que como le digo es más adjetivo que sustantivo

y que podamos hacer una ley a la altura de este país y de la experiencia que además nosotros porque euskadi es modelo en transparencia en muchos sitios y se utiliza de referencia en muchos países por lo tanto no tenemos que perder ese punch que tenemos

por lo tanto espero que tengamos un debate interesante y vivo y que consigamos una ley
a la altura de lo que merecemos y se merecen los ciudadanos vascos nada mas y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea